muchas gracias señora presidenta señorías el partido popular el grupo popular no es la primera vez que lo hace y que lo dice

defiende una formación integral para las personas una educación en valores una escuela que eduque en valores en el que se desarrollen todas las dimensiones de la personalidad

de los alumnos vascos también esa dimensión trascendente y religiosa

el grupo popular interpeló a la consejera uriarte sobre el tratamiento de la religión en la escuela pública vasca volvimos a preguntarle por las campañas

se ponen en marcha para condicionar la voluntad de las familias para condicionar la voluntad de las madres y padres a la hora de matricular a sus hijos a la hora de solicitar la asignatura de religión en los centros públicos de nuestra comunidad carteles en centros públicos cartas a los padres circulares de las apas campañas orquestadas dirigidas desde

federación de padres de la escuela pública subvencionada con fondos públicos pero incluso

pero a la vista de nuestra interpelación la consejera

ninguna de esas situaciones ninguno de esos hechos ninguna campaña de

la voluntad de las familias tampoco le constaba al parecer a la consejera que se estuviese incumpliendo la ley que en muchos centros se imparta

la asignatura de religión fuera del horario escolar

no se oferta la asignatura alternativa la llamada debida atención educativa se ofrece

refuerzo en ciencias en matemáticas en inglés incluso en algunos caso horas de estudios refuerzan el aprendizaje lo que claramente

supone una clara discriminación y perjudica claramente a los alumnos que optan por la religión la consejera aseguró entonces en sede parlamentaria que el departamento de educación había dado que ha dado pasos necesarios para garantizar leo textualmente palabras de la consejera el departamento ha dado todos los pasos necesarios para garantizar el derecho de las familias a que sus hijos e hijas reciban la debida formación religiosa y siempre desde el máximo respecto al principio de igualdad

sin que esta circunstancia pueda suponer discriminación alguna pues bien yo creo y vuelvo a manifestar aquí que la realidad es otra

nos da la sensación que ha actuado forzado por los acontecimientos y siempre a remolque de los mismos

de hacer cumplir sus propias instrucciones sin la voluntad de estar vigilante a sabiendas de que hay un empeño constatado por parte de sindicatos y algunas asociaciones de padres de sacar la religión de la escuela y por ende

conculcar el derecho de padres y madres y también de los alumnos a elegir libremente

pero no para hablar y para discutir por enésima vez sobre la religión en la escuela no queremos traer el debate aquí de religión sí religión no es un debate ya superado y además

por hacer efectiva ese derecho de los padres este es un debate

si se tiene o no que cumplir la ley si el departamento tiene que estar vigilante o no en el cumplimiento de la ley

es capaz de reclamar una vez más que se cumpla la ley y que se garanticen y se respeten los derechos

la posibilidad de elegir como le garantizan nuestra constitución y nuestras leyes la posibilidad de elegir la religión en la escuela pública ese es el debate el debate

si de verdad vamos a garantizar que para que no haya ninguna discriminación se va a resolver de una vez por todas que en los centros públicos

de manera optativa religión o una asignatura alternativa la que hoy se llama de vida atención educativa pusimos ejemplos

los grupos directivos se están ocupando de comunicar a las familias desde la ventanilla del propio centro o por vía telefónica según han denunciado también algunos padres que en su centro escolar nadie puede apuntarse a las enseñanzas en religión puesto que

y sigue pasando se comunica a las familias que el claustro ha decidido que en ese centro no se oferte religión o porque nunca se ha dado la religión en ese centro se explica en por escrito o porque

no ofertar la religión que están obligados a ofertar esa asignatura que están obligados por la ley a ofertarla o en algunos casos hemos asistido a hechos como que

la que en circular a las familias pide que las familias no elijan la religión pusimos algunos ejemplos pusimos ejemplos como los de salburua en vitoria cuando los padres llegaron a

se les dijo directamente que no se daba y se les hizo cambiar in situ su elección en la ikastola umandi

a usted donde directamente se dice que nunca se ha dado

la religión su hija estará sola este caso que usted no conocía donde

se vuelve a dar en ese centro una clara campaña año tras año curso tras curso por parte de entre otros

con fondos públicos lleva a delante campañas entre las familias para sacar la religión fuera del horario lectivo por una escuela laica decía su campaña campaña pública

lectivo bien hoy puesto que la consejera decía que no le constaba

ejemplos concretos en los tres territorios porque hay quien ha hecho un informe pero es que además se lo han traslado a ustedes nos consta además que son

de educación por ejemplo en álava en llodio centro laudio la asignatura no se imparte

no optan por la religión en segundo se van a casa todos porque no se oferta la religión en el centro aniturri salvatierra

curiosamente cero alumnos en primero cero alumnos en segundo no se oferta la religión nadie la cursa y nos preguntamos

cuál es la alternativa la asignatura alternativa que se da ninguna los alumnos se van a su casa

cursan ningún tipo de alternativa pero podemos ir siguiendo el koldo mitxelena de vitoria casualmente en primero

tres héroes de ciento cuarenta y cinco alumnos cursanla religión en segundo por supuesto cero de ciento sesenta porque no se oferta en primero la religión está fuera del horario escolar la dirección les ha dicho que solo cuando

pueden acudir al centro y eso consta en el omr del centro desde luego en segundo nadie se va a casa nadie acude a la

nadie le acusa y tampoco hay alternativa en el horario lectivo mendebaldea cuatro alumnos en primero dos en segundo los alumnos que no cursan la religión se van a casa consta en el

solicitó que la dirección autorizase a los alumnos a los grupos poder irse a casa porque además se coloca la hora de religión la última del horario del día en el centro ramiro de maeztu ya aquí con pruebas para que la consejera se las vamos a entregar

no se oferta la religión pero es que además ni siquiera se ocupan de explicar a los padres que no la elijan no no aquí directamente

en el impreso de matrícula que no es el mismo que cuelga en la web del departamento en la que efectivamente se especifica que los centros tienen que

proponer en optativas religión o alternativa a la religión

pero esto no es lo que pasa en ese centro lo que pasa en ese centro es que se entrega esta esta otra y está en la web la web del centro y aquí ni en primero ni en segundo de bachillerato

y mucho menos la alternativa a la religión no existe eso está pasando hoy eso está pasando hoy pero nos podemos referir

nos podemos referir a bizkaia donde efectivamente en derio ni se oferta la religión ni la alternativa en gernika ni se oferta la religión ni la alternativa se van a casa sí en primero en un

se van a casa y los padres semanalmente justifican las faltas se coloca la religión fuera del horario escolar de tres y media a cuatro y media el resto

se van a su casa antes que los que cursan religión eso está pasando en muchos centros

es de asistencia obligatoria fuera del horario escolar en la hoja de matricula se dice que la religión es de asistencia obligatoria fuera del horario escolar y que el que no cursa la religión se puede ir a su casa bueno pues así están las cosas fray

durango se van a casa hay dos alumnos

pero la religión fuera del horario escolar de tres y media a cuatro y media y en segundo ni siquiera se oferta por supuesto

en primero se van a su casa no hay asignatura alternativa podríamos

lo mismo la alternativa no se cursa se van a su casa bueno esto es lo que está pasando

podríamos hablar de gipuzkoa vamos a señalar uno el

uno de los centros más grandes de san sebastián bueno pues la religión está fuera del horario escolar los alumnos se van a casa

bien a nosotros señora consejera señorías eso nos parece discriminar

nos parece que el departamento en este caso no está cumpliendo con su obligación y ya sabemos

que claramente se van a oponer a que nosotros defendamos el derecho de las familias nos preguntamos qué va a hacer el pnv

a garantizar el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos si el pnv está dispuesto a garantizar esa voluntad de muchas familias a elegir la religión dentro del horario escolar en la escuela pública vasca

a favor o va a mirar para otro lado mientras hay campañas claras y contundentes que quieren sacar la religión de la escuela pública vasca y convertir

a la escuela concertada dejar a la escuela pública

para las familias creo que s empobrecer la escuela pública empobrecer y debilitar a la escuela pública desde luego nosotros queremos llamar la atención

sobre ello impedir o coaccionar a las familias a que puedan ejercitar ese derecho va contra la legislación vigente pero es que va además contra marco de convivencia que deberíamos construir en esta sociedad creo que asumir lo dije ya el otro día asumir con normalidad

de educación religiosa creo que debe ser asumido con naturalidad se me acaba el tiempo lo podré hacer en mi segunda intervención vamos a hablar también de lo que está pasando en europa a algunos

como ejemplo a seguir nosotros vamos a hablar de lo que pasa en europa desde luego

creo que es de justicia reclamar aquí también ese derecho en la escuela vasca en la escuela pública vasca para las madres y padres que quieran ejercer en libertad ese derecho

pero lo que para usted es un debate superado para este grupo

del debate por lo tanto lo que hay que debatir o no hay que debatir lo decidirá cada cual eskolan guretzat ikasle guztiak

a decidir libremente la educación de sus hijos y de sus hijas quieran instruirlos y así lo decidan en una creencia determinada pueden llevarlos

que son los lugares adecuados para recibir dicha instrucción eta funtsean

eskola laikoaren alde dago la legislación actual en materia educativa

recoge y podemos decir que sobrepasa lo dispuesto en el acuerdo

y asuntos culturales que no es más que un desarrollo del concordato firmado entre españa y la santa sede

según esta legislación los centros tienen que ofertar la asignatura de religión y los padres y madres o alumnado decidir si quieren cursar o no

hay desconfianza hacia la comunidad educativa en todas las palabras en cada una de las que dice

sí gracias presidenta buenos días en primer lugar quiero decir que nosotros

del partido popular respetamos lo que se nos propone desde el partido popular respetamos las ideas políticas del señor oyarzabal

sus posibles creencias religiosas respetamos todo eso y también quiero decir en segundo lugar que nosotros no queremos que ninguna ley se incumpla y queremos decir también que nosotros no queremos que haya ningún tipo de amenaza ni campaña ni ningún tipo de boicot o presión para cercenar el cumplimiento

el señor oyarzabal ha puesto una serie de ejemplos en relación a este asunto supuestas amenazas campañas

o diferentes tipos de presión para que las familias no puedan elegir la clase de religión nosotros no queremos que se incumpla la ley y queremos que en general se cumplan las sentencias de los tribunales queremos que se cumplan las leyes

o al menos no proponemos incumplirlas directamente dicho esto nosotros hemos querido defender con nuestra enmienda algo que para nosotros es una cuestión

el laicismo nosotros pensamos que a más laicismo más democracia y no se puede hablar de democracia plena

la configuración de un estado verdaderamente laico ya digo a más laicismo

que es semejante a la que en otras ocasiones hemos presentado también en este parlamento incluso hemos firmado enmiendas transaccionales con algunos otros grupos proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa a abordar la revisión del acuerdo entre españa y la santa sede sobre enseñanza y asuntos culturales

proponemos instar al gobierno de españa a dar pasos hacia la necesaria consecución de un estado verdaderamente laico es decir un estado realmente ante todas las creencias religiosas respetuosas con los derechos humanos y proponemos que este parlamento

y se comprometa a él mismo a defender una escuela laica

de ninguna religión las creencias religiosas de cada cual deben mantenerse en el ámbito privado y personal de cada cual

superado como ha señalado el señor oyarzabal ni mucho menos es un asunto pendiente la configuración de un estado laico es un asunto pendiente que nosotros seguimos reclamando pensamos que laicismo y democracia están íntimamente relacionados por tanto

nuevamente la enseñanza completamente laica sin ninguna clase de religión la escuela no está para eso la escuela no está para que se den clases de religión no es esa la función de la escuela para eso están las mezquitas las iglesias

las creencias religiosas de cada cual deben mantenerse en el ámbito privado y personal de cada uno es cosa de cada cual y el estado debe mantenerse ante todas ellas un estado democrático por lo tanto tiene que ser laico es decir ante todas las creencias religiosas respetuosas con los derecho humanos y con nuestro sistema jurídico y también ante la creencia de los que no creen en religión alguna más allá del número de creyentes o no creyentes que haya en la sociedad

o no reivindicamos una escuela en cuyo seno no se imparta religión no donde se impartan todas por cierto como algún despistado ha propuesto en este parlamento en alguna ocasión sino donde no se imparta ninguna eso es defender una escuela laica la posición nuestra no es antirreligiosa sino laica se deben transmitir

pero no clases de religión no creencias religiosas ya digo que esto es cosa de cada uno en la escuela pública no deberían darse cursos de ninguna religión lo mismo que tampoco deberían ofrecerse lecciones

por tanto ni clases de religión ni lecciones

esto es lo que siempre hemos defendido y lo que volvemos a defender hoy defendemos lo que a día de hoy no está vigente ni en el conjunto de españa ni obviamente

el laicismo en mayúsculas respetamos la legalidad vigente actual pero

la enmienda que nosotros hemos presentado gracias eskerrik asko

respaldó abiertamente dos resoluciones una a propuesta del grupo socialista que decía el parlamento vasco considera

y del horario escolar común a todo el alumnado la segunda a propuesta de upyd que decía el parlamento vasco rechaza la introducción de la religión evaluable

ideológico o identitario es claro señorías que este parlamento respalda esas posiciones

esas posiciones son las que querríamos tener

tenemos que llegar a ellas con la legislación vigente el debate que hoy trae aquí el señor oyarzabal obviamente respetable y además

ciertamente es un debate de los hechos ya pusimos nosotros

cuando este gobierno vasco modificó el decreto de bachillerato

en una orientación que hoy se demuestra impracticable porque no se puede obligar al noventa y siete por ciento de una comunidad a hacer algo que no quería y que no debía hacer si no

hubieran elegido otra cosa y este es el problema el problema es que para hacer practicable lo que el gobierno vasco ha puesto en su

lo que es la competencia la autonomía de organización de un centro educativo

no puede ser por eso me han interesado mucho los casos que ha traído aquí el señor oyarzabal

no incumplen estos y otros muchos más estos y otros muchos más están en lo que estaban es decir en una situación en la que en bachillerato

era de oferta obligada para los centros pero ciertamente no estaba dentro del horario ni el currículum escolar al menos dentro del horario al menos que el centro lo quisiera así por tanto señor oyarzabal mi grupo no podrá su posición hoy aquí por varias razones primero porque está radicalmente en contra de la interpretación que ha hecho este gobierno su departamento de educación política lingüística y cultura con respecto a la sentencia del tribunal supremo una interpretación entre otras muchas pero había alguna otra

que habría permitido que las cosas siguieran

segunda cuestión señor oyarzabal a qué legislación se refiere usted yo a otra persona no se lo diría pero claro

de qué legislación vigente nos habla ahora porque he de recordar

a la que usted defendió aquí apenas hace unos días afirma la religión no es ni siquiera de oferta obligada

que es una optativa no sé cómo la administrarán porque las optativas en bachilleratos suelen tener cuatro horas no sé ni cómo la van a administrar esta es otra de las

cuando uno va al terreno concreto pero es una optativa por lo tanto ni siquiera de oferta

una opción para el alumno que desde luego no se va a corresponder con ninguna asignatura espejo

por tanto tenemos una lomce que va más allá que más en religión en libertad que lo que tenemos en el decreto de este gobierno que habrá que modificar

es doble la discriminación es para aquellos alumnos y alumnas

ahora no van a poder cursar educación para la ciudadanía porque han optado por la religión

y discriminación también para el otro noventa y siete por ciento que por razones sobrevenidas

religión tienen que permanecer en el centro cuando tienen una carga de trabajo lectiva etcétera para que alguien les cuide gasto en ese tiempo absolutamente discrecional al que se ha dado llamar o estudio o estudio asistido mire usted ha sido precisamente el abuso de la jerarquía eclesiástica española

el ejercicio en el abuso de la jerarquía española la que nos ha llevado

porque la religión efectivamente tal y como se contiene en los acuerdos

un año después de la constitución con una españa diferente cuando ha habido una evolución de la conciencia social del pensamiento en la cultura social

cuando todo eso ha sucedido sin embargo en el setenta y nueve solo se firma un derecho aquel que quiere religión la pueda hacer han sido los distintos recursos puestos a los tribunales por la propia jerarquía

la que los ha llevado a asignatura espejo la que los ha llevado a todo esto que es impracticable

este parlamento pienso en su casi mayoría quiere moverse

laica hacia un currículum laico hacia una posición en la que la religión no aparezca en el horario escolar de los alumnos

que la escuela es un espacio público organizado y que además puede llegar a ofertar y ayudar a las religiones distintas aportando

pero de ninguna de las maneras puede estar eso en un horario para todos ni en un currículum escolar y mucho menos ser evaluable y mucho menos valer pasar con nota superior y mucho menos para una beca por tanto cuando uno cuando un grupo político se quiere mover de una posición a otra efectivamente tiene que hacer dos consideraciones una que tiene

por la que quiere empezar a modificar el marco nosotros estamos al comienzo del debate estamos en la filosofía de fondo y por lo tanto esa filosofía es la que tenemos que hacer prosperar para llegar a la modificación legislativa

es decir concretamente el grupo de upyd representa reproduce las resoluciones que

ha asumido en su conferencia de madrid y además ha planteado o va a plantear o está planteando ya como debate de fondo en el congreso de los diputados

se denuncie los acuerdos con la santa sede por qué porque son impracticables porque no se corresponden con la realidad social y cuando la ley no se corresponde con la realidad social es obligación de los poderes públicos intentar modificarla y mientras no se modifique hay que cumplirla

y en segundo lugar efectivamente hay cuestiones más concretas que ya representamos la semana pasada y que hoy vuelve a traer aquí el grupo de bildu

movámonos hacia una escuela laica bien en ambos casos yo pediría si eventualmente llega al punto de poderlos votar

porque hay alguna cuestión en ambas propuestas con las que no estaríamos de acuerdo

pues tendremos algunos momentos de consenso muchas gracias

hay una sentencia del tribunal supremo y esa es la realidad a la que debemos de atender hoy en día y que ya se ha atendido por parte del gobierno vasco el gobierno vasco no ha hecho sino cumplir el marco legal vigente que es lo que pide el partido popular en su primer punto de su texto de su moción que estamos debatiendo y todo lo que el actual gobierno ha hecho lo explicó a la perfección la señora consejera en contestación a su

ezin lukete hori ezkutatu zeren religión sí o religión no señor oyarzabal

no se ha superado y se ha visto en los discursos que me han precedido en el uso de la palabra de los diferentes grupos la exconsejera de educación la señora

le decía hace quince días a la actual consejera y lo ha vuelto

a su forma de ver muy poco imaginativa para poder haber sorteado la sentencia sí para haberla podido sortear al mismo tiempo le avisaba también que el departamento estaba actuando con una escasísima seguridad jurídica enviando únicamente una circular

escasísima seguridad jurídica supone hacer las cosas mal y no es precisamente lo que este departamento ha hecho o acaso contaba usted su departamento con informes favorables de los servicios jurídicos

aplicar la sentencia le recuerdo que el actual departamento tuvo que iniciar una nueva modificación del decreto de bachillerato porque el que ustedes dejaron tramitándose no contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos eso sí que podemos llamarle

total y absoluta seguridad jurídica el departamento aparte de asegurar una seguridad jurídica envía una circular a los centros proponiéndoles además cinco vías de puesta en marcha para la alternativa que se iba a ofrecer al alumnado que no optara por la asignatura de religión en cambio el señor oyarzabal

en un sentido totalmente opuesto claro está reconocía eso sí al departamento

centros se estaban dando situaciones de presiones hacia aitas hacia amas y que por parte del departamento exigía un mayor control en esos centros que hoy nos ha traído también a modo de ejemplo por parte del departamento son totalmente desconocedores porque no es cierto que haya llegado ni a manos de viceconsejera ni a las inspecciones de cada uno de los territorios esos ejemplos

que el propósito único propósito del departamento de educación es el de garantizar el derecho a las familias para que sus hijos e hijas reciban puedan recibir

de acuerdo con sus propias convicciones porque eso es lo que está establecido así lo dice la ley de escuela pública vasca este fin se llevará a cabo desde el máximo respeto y cumplimiento del principio de igualdad por ello este gobierno aboga por un sistema educativo no confesional basado en criterios de objetividad tolerancia y neutralidad que garantice la libertad de elección de las personas y la no discriminación por raza o religión cuando el nuevo departamento vio necesario

del decreto puso en marcha muchas medidas que son las que la consejera ya explicó en su intervención y que no quiero repetir hoy por no alargarme todo lo que la consejera explicó señor oyarzabal y que también achacó usted al gobierno por qué

en poner en marcha esa sentencia esa aplicación de esa sentencia

ha hecho no se ha hecho en dos días ha sido necesaria una serie de reflexiones

un trabajo muy extenso muy denso que no ha sido posible hacerlo como usted decía en un espacio breve de tiempo por lo que el departamento ha necesitado su tiempo sus reflexiones para poder trasladar a los centros cuál debía de ser la mejor o trasladar propuestas de cuál debía de ser la mejor propuesta para poder aplicar esa sentencia

eta volviendo al partido popular nos ha presentado una moción que no

un segundo punto ya que la sentencia en sí como le he dicho está cumplida más que cumplida pero en su segundo punto de la moción para dar cumplimiento al segundo punto de la moción creemos que ya existe suficientes vías de comunicación entre el grupo popular y el gobierno

de una proposición no de ley ya sin entrar

grupo upyd que pasa de utilizar un debate sobre la aplicación de una sentencia para pedir que se rompa el acuerdo estado iglesia cuyo recorrido creemos que como propuesta pudiera estar en otros ámbitos que no corresponde al parlamento vasco en definitiva la moción

sobre si se cumple la sentencia el gobierno o no

no ha tenido en ningún momento discusión alguna las sentencias nos gusten o no están para cumplirlas dejando también de lado las apuestas imaginativas ha propuesto que debieran de existir apuestas imaginativas para poder abordar la legalidad por las que al parecer apuesta en este caso el partido socialista aún así necesita estabilidad y eso es lo que este gobierno busca actualmente debemos garantizar el derecho de no unos pocos alumnos a obtener una educación en religión y con el objeto de no discriminación o supuesto como baluarte

una educación religiosa que son bastantes más para que puedan tener una alternativa lectiva que les capacite en otras materias y desarrolle su competencia

las personas máxime cuando hay una sentencia de por medio que así lo recuerda según los datos de matriculación del curso actual

señora consejera hay mil ochocientos sesenta alumnos y alumnas de bachiller que han optado por cursar religión mientras que son cuatro mil novecientos cincuenta y dos los que se han decantado por cursar la alternativa

selectivas entre una opción y otra yo y mi grupo nos quedamos con esos aitas y esas amas que hemos podido oír en los medios de comunicación que

injusta porque buscan una educación pura y dura para sus hijos y sus hijas lanzan han lanzado un compromiso a la sociedad en positivo

en competencias del alumnado que opte por esta asignatura y con algo más también me quiero quedar con la garantía de respeto como herramienta de convivencia

muchas gracias señora presidenta señorías

documento a la consejera que prueba efectivamente que una cosa es el impreso que teóricamente debería ser oficial

entregan a las familias a rellenar esa es la prueba con el sello del centro y del gobierno vasco con el membrete en el propio documento

no quería que este debate fuese un debate sobre si religión sí o no en la escuela vasca que ya lo hemos tenido en otras ocasiones sino que quería hablar de legalidad

cuál es su posición en relación con la oferta alternativa a la religión ustedes no quieren la religión en la enseñanza pero tampoco tienen claro que quieran nada más

obligatoria en buena parte de los países europeos en alemania

es un país que no le interesa nada a la señora celaá porque no es un ejemplo para nosotros pero grecia

los países del norte esos en los que la señora celaá siempre dice que debemos fijarnos pues la asignatura de religión es obligatoria en dinamarca en finlandia

en reino unido y en suecia también en luxemburgo no son democráticos tienen algún pero se le puede poner un pero es una democracia devaluada por esta razón

en finlandia país ejemplar la asignatura de religión

es de obligatoria oferta y los padres que no quieren desde hace unos años

no que se vayan a su casa en finlandia religión o asignatura alternativa en españa

pero claro hay que optar entre religión u otra cosa bélgica españa holanda irlanda italia portugal como nosotros tienen

me dice a qué ley oiga pues a la sentencia del tribunal supremo

pero hay una sentencia del tribunal supremo de julio del dos mil doce que como el otro día expuse es muy clara

deberán cursar una alternativa una asignatura alternativa la que llaman la debida atención educativa

esto es y en función de esa sentencia el gobierno vasco tarde y mal pero lo han hecho en abril del dos mil trece

establece una resolución que dirigía a los centros en julio otra vez una

dice comunica que hay que cumplir a los centros pero comunicar que hay que cumplir no es cumplir nuestra propuesta señora corrales no dice que el gobierno diga que hay que cumplir el gobierno debe hacer cumplir hacer cumplir

lo que le pedimos es que haga cumplir la normativa y sobre todo que no permita ningún tipo de incumplimiento y discriminación en los centros y le estamos diciendo a pesar de que ustedes niegan

y los responsables del departamento lo saben porque los profesores de religión lo están denunciando señores de eh bildu y upyd

enseñanza religiosa con la catequesis con el culto pero creen que ir a una clase de religión es como ir a misa pero usted es profesora

usted venir a esta tribuna a decir que ir a clase de religión es como ir a misa que comparar la clase de religión con la catequesis con el culto religioso

a las familias justifican que determinados sindicatos impongan sus prejuicios ideológicos en la escuela a la mayoría están tratando además de justificar

de religión nosotros reivindicamos el trabajo de esos profesores

veníamos aquí a tratar de ver cuál es su alternativa la debida atención educativa en nuestra opinión tiene que proponer objetivos útiles y claros se les llenaba la boca reclamando la asignatura

y ahora ustedes no quieren no quieren aprovechar esta oportunidad para una educación en valores éticos cívicos democráticos que los alumnos conozcan la cultura la historia de las religiones pero qué es este país qué es europa

cómo construyen su visión del mundo y de lo que somos nosotros como país sin conocer la historia de las religiones pero no es una oportunidad

poder optar por una asignatura que pueda definir objetivos claros una programación

los contenidos que se quieren impartir y por supuesto plantearme todos de evaluación

y le preguntamos al pnv cuál es el problema cuál es el problema
de hacer cumplir esto oyarzabal jauna amaitzen joan mesedez termino ya señora presidenta cuál es el problema para que haya una asignatura y cuál es el problema no solo de hacer cumplir esto sino la segunda parte de nuestra moción

que este departamento si dice desconocer que estas cosas están pasando pueda presentar aquí un informe en el plazo de unos meses diciendo qué está ocurriendo en cada centro cuántos alumnos cursan cuántos no cursan

la asignatura alternativa qué problema hay en trasladar esa información al parlamento o quieren seguir mirando para otro lado y eludir sus responsabilidades nada más y muchas gracias

esatera es una clara imposición señor oyarzabal

y se tenga que organizar todo el centro y el currículum de todo el alumnado en función de esas clases de religión católica además solo básicamente

se suele esgrimir además que la religión aporta una educación en valores

pero no nos engañemos en la escuela siempre en valores los valores no son monopolio de ningún grupo ni de ninguna creencia religiosa el asunto está en qué valores

que sean ejes de convivencia de sociedades como las actuales cada vez más diversas y cada vez

bidegabea eta inposatzailea da inolako zalantzarik gabe no es cierto y estoy convencida de ello y como bien ha dicho usted porque llevo muchos años en la enseñanza también de que haya amenaza en los centros para que no se pida religión ni impedimento

por parte de ello por eso anteriormente ya le he dicho que la desconfianza que está mostrando y la falta de respeto hacia la comunidad educativa

ahora bien yo creo que un consejo escolar una dirección tiene también no solamente el derecho sino sobre todo el deber

se le informe de lo que en ese centro se está haciendo de la trayectoria que tiene de las razones para ello hasta ahí y no hay más lo otro es lo que ustedes quieren inventarse para no sé muy bien qué y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir

no confundamos historia de las religiones se da hoy en día también incluso para aquellos y aquellas alumnas que no eligen la asignatura de religión

eso se tiene que hacer y otra cosa son las creencias religiosas de cada uno y de cada una y esas están mucho mejor

defendemos la escuela laica eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea

gracias presidenta es que no sé si merece la pena decir que

a los creyentes porque en el fondo no tiene absolutamente nada que ver se puede ser creyente y se puede defender a la vez una escuela pública laica se puede ser creyente y se puede defender el laicismo hay millónes de creyentes en españa

porque eso debe situarse en el ámbito privado de cada uno esto se entiende perfectamente bien

los hay creyentes entre los militantes de upyd los hay creyentes y entre los votantes obviamente también y muchos pero este asunto lo entienden perfectamente como un paso para perfeccionar la democracia porque creo

mejor democracia lo he dicho antes y lo reitero se entiende perfectamente bien

perfectamente bien pero entienden también perfectamente que las creencias religiosas de cada uno son asuntos particulares y no debe introducirse este asunto en la escuela porque eso es imponer

una determinada manera de pensar o una determinada creencia religiosa usted hablaba de imposición la imposición es esa son ustedes los que están

al conjunto de la población son ustedes lo han venido haciendo durante treinta años también el partido socialista obrero español lo ha venido haciendo por mucho que ahora parece ser que defiendan algo distinto en el fondo son ustedes

este modelo y este estado que es cualquier cosa menos un estado verdaderamente laico por lo tanto son ustedes los que están imponiendo y los que han venido imponiendo determinadas creencias religiosas o pretendiendo imponer determinadas creencias religiosas al conjunto

imposición tener que elegir entre religión católica u otra asignatura es discriminación es imposición no es ninguna oportunidad es una

copiar lo bueno y no lo malo hay que intentar analizar qué es lo que hace cada país

podemos echar la vista a francia a la laica francia y podemos elegir lo mejor de cada uno de ellos y copiar siempre lo mejor no copiar lo que únicamente nos interesa por cierto y creo que es algo importante

de la iglesia católica la principal responsable de que no tengamos o disfrutemos de un estado verdaderamente laico lo principal no ha sido la presión

los principales responsables han sido el partido popular y el partido socialista obrero español que no han hecho nada para cambiarlo

y el partido socialista obrero español tampoco ha hecho nada

ni cree en ello porque han estado gobernando largos años y nunca se ha hecho nada por lo tanto no echemos la culpa siempre al resto y en este caso a la iglesia católica siempre digo que son los partidos políticos los representantes políticos

los últimos responsables de que se apliquen unas políticas u otras o de que se modifiquen determinadas leyes o que se tomen determinadas decisiones estamos acostumbrados a que se diga que los poderes económicos obligan a los distintos gobiernos a tomar unas decisiones u otras

es falso son los partidos políticos son los representantes de los ciudadanos son los ciudadanos realmente los que pueden cambiar las cosas no busquemos por lo tanto

una presión por parte de la iglesia católica o en concreto de la jerarquía de la iglesia católica son excusas son los representantes de los ciudadanos

la capacidad suficiente para cambiar las cosas y no se ha cambiado esto y por lo tanto es un asunto pendiente popular y partido socialista han gobernado prácticamente siempre y no propusieron nunca cambiarlo esa es la realidad nosotros en nuestros siete años de vida lo llevamos defendiendo y lo seguiremos defendiendo y en cuanto pretensión o a la intención del partido socialista de votar por puntos nosotros no tendremos ningún problema aunque me gustaría saber cuál de los puntos

el tercero de sus puntos por la razón de que nosotros pensamos que la escuela puede ser aprovechada para ayudar

no en horario escolar no dentro del currículum pero sí

espacios para que extra curricularmente pueda ser utilizada esta es una de las cuestiones más demandadas por algunas confesiones religiosas

la escuela pudiera prestar ese servicio por cierto como hace en muchos lugares europeos por lo cual

llevada a confusión por algunas fuerzas políticas aquí para afirmar

diferente completamente diferente porque es verdad que la religión las religiones las confesiones habitan muchas escuelas pero ciertamente

no como materia evaluable y desde luego nunca como confesión sí como historia de las religiones como aquí se ha dicho cuando es evaluable para ser evaluada obviamente tiene que aportar lo que es un terreno más común más propicio y desde luego efectivamente tenemos ejemplos de todo tipo porque en fin en francia no se permite ni siquiera el velo por tanto

su propio progreso lleva su propio camino y en este el camino que vamos llevando es este y por qué por que la religión hay que practicarla

y la religión también y en esto también discrepo con upyd que ya veo que discrepa también con el partido popular y el partido socialista en otras cosas pero ciertamente la religión no solamente es un asunto privado señor maneiro la religión también el hecho religioso es un asunto público

religiosas de las que tienen que tomar decisión las distintas administraciones públicas podemos hablar de los comedores escolares desde los comedores escolares hasta centro de culto comidas quiero decir es decir hay cuestiones que afectan a las confesiones y de las que tienen que tienen que tomar decisión los poderes públicos por tanto es verdad que en cuanto a creencia en cuanto a fe

llegar a un acuerdo pero en cuanto a lo que significa la gestión en la comunidad la gestión del culto etcétera también afecta a los poderes públicos

son cuestiones delicadas por eso este debate y otros pero creo que podríamos llegar a concluir ciertamente que la laicidad debiera ser el punto de llegada

yo sí también lo decía el otro día en el debate no es anticlericarismo es justo lo contrario es decir la laicidad es el punto de encuentro de toda la ciudadanía piense como piensa tenga la fe que tenga y esto a mi me parece de gran importancia

ciertamente o sea es el camino que hemos de recorrer y si tenemos una legislación pero queremos tener otra filosofía tenemos que modificar esa legislación y hay que hacerlo

por aplicar de manera inmediata y además en un sentido y he de decir que también tenía otras interpretaciones también con seguridad jurídica por que vamos a ver ahora qué ocurre qué el grupo nacionalista vasco conoce cuál es la seguridad jurídica de una posibilidad de interpretaciones múltiples

esta también tendría seguridad jurídica pero me sorprende y quiero decirle que ustedes tengan tal devoción por la aplicación

de julio de dos mil doce en materia de religión y sin embargo no hayan tenido ninguna en la misma sentencia en otra sentencia del tribunal supremo también de verano de dos mil doce relacionada con la educación diferenciada me sorprende sobremanera

sobre manera por tanto oiga eso no sé si será seguridad jurídica o inseguridad jurídica pero desde luego lo que es es una incoherencia como una piano

concluyendo el grupo del partido popular tiene todo el derecho a recibir la información que solicita por esta propuesta la puede hacer por pregunta o por solicitud de información documentada

en segunda conclusión el gobierno habrá de ver porque el gobierno no ha mandado ninguna indicación a los centros educativos de cómo debería cumplir

qué hace con ese decreto que se le ha quedado cuya sentencia y cuya modificación se le ha quedado absolutamente obsoleto en el tiempo y que es impracticable y en tercer lugar

quiero pensar que este parlamento en su mayoría quiere avanzar hacía una escuela laica siempre cumpliendo la legislación vigente pero
tratando de modificarla y nada más muchas gracias eskerrik asko

hemos entendido muy bien qué es lo que dice el punto número uno de su moción exactamente que el gobierno

hace cumplir primero la ha cumplido él y la está haciendo cumplir todas aquellas intervenciones que debe hacer por que así se lo requieren alumnos alumnas familiares aitas amas asociaciones así lo está haciendo pero tal y como dijo la señora consejera

una única intervención es la que la inspección ha tenido oficialmente y le vuelvo a repetir

a este lugar oficialmente no lo dispone ni la viceconsejera de educación ni la propia consejera por lo que

se lo ha remitido lo hagan remitir al gobierno porque encantado estará el gobierno el departamento de educación más concretamente en poder dar una salida que usted tiene en sus manos y el gobierno no lo tiene el gobierno ha cumplido la sentencia y ha puesto todas las medidas para hacerlo lo mejor posible como bien le ha dicho también la señora consejera en lo que usted pide la señora

lo que usted pide en su segundo punto tiene otras vías mejor que a través de una proposición no de ley al partido socialista

esta también esta solución también tendría seguridad jurídica pero qué solución la que usted planteó señora celaá cuando usted estaba en el gobierno y propuso como modificación del decreto de bachillerato que no contaba

el favorable informe de los servicios jurídicos no señora celaá el actual consejo el actual gobierno y departamento de educación se encontró con informes desfavorables

a hacer una modificación nueva del decreto atendiendo así a lo que la sentencia

esta sí que tiene sí que cuenta con los informes favorables de los servicios jurídicos del departamento de

va a votar a favor de los dos primeros puntos de la moción de la enmienda de totalidad que ha presentado el grupo eh bildu es decir

por que la religión desaparezca no entendemos qué ha hecho usted qué hizo en su momento cuando el partido socialista gobernó

por qué no tomo medidas por qué no modificó que estuvo en sus manos por qué no modificó en este caso el

necesarios o igual es que esa necesidad la ve ahora que usted está en oposición y en cambio cuando está en gobierno cuál es su obligación que no es sino otra que cumplir las sentencias de obligado cumplimiento y es lo que este gobierno está haciendo por lo tanto lo que este gobierno ha hecho cuenta con los informes favorables de los servicios jurídicos cosa que no contaba la propuesta que usted hizo hacer a su departamento cuando usted era consejera o también va usted a apoyar la mayoría de los puntos de la moción del texto alternativo enmienda de totalidad del partido popular pero dónde queda

presidente zapatero o el partido socialista en su momento estuvo elaborando

creo que denominada libertad religiosa ley de libertad religiosa pero que no llegó nunca al congreso

en el gobierno de españa ustedes tuvieron también la oportunidad de hacerlo pero se quedó en agua de borrajas señora celaá qué diferente es estar en gobierno y ver qué es de obligado cumplimiento y qué diferente es estar en oposición y al grupo de eh bildu al igual que la ha solicitado la señora celaá

se pudiesen votar su texto su texto alternativo por puntos y para terminar

la legalidad por un lado como nos lo deja entrever el partido popular así como no espero tampoco que este parlamento pida al gobierno que incumpla por otro lado

suficiente para cumplir la sentencia y al mismo modo sí al mismo modo acompañó a los centros con cinco propuestas para cómo debía de aplicarse o cómo recomendaba el propio departamento que debía de aplicarse la asignatura

educativa por lo tanto creo que el gobierno ha cumplido con su deber y ha hecho cumplir una sentencia de obligado cumplimiento eskerrik asko

eta bitartean kontrako norabidean doan politika egiten du consejeros y consejeras de este gobierno

otros hablan también de la excelencia de nuestros servicios como el consejero de sanidad incluso se atreven a felicitar

y no estaría mal si todo eso no tuviera un reverso amargo

uno detrás de otro hasta hacer temblar los bolsillos de los trabajadores públicos con bajadas que rondan el veinticinco por ciento de su poder adquisitivo

y ha sido reiteradamente solicitada en este parlamento bajada drástica de las sustituciones amortizaciones de puestos de trabajos

ejemplos varios y diversos de lo que es no hacer una política real

sí gracias presidenta hace aproximadamente un mes hace varias semanas

parlamento una iniciativa de upyd que pretendía criticar la congelación del sueldo de los empleados públicos habida

el sueldo de los empleados públicos de cara al año dos mil catorce y evidentemente una crítica también no solo a las congelaciones habidas sino incluso a las reducciones salariales

lo injusto de las congelaciones salariales medidas impulsadas por distintos gobiernos en los últimos tiempos medidas y recortes sociales impulsados por los distintos gobiernos españoles que obviamente también han tenido repercusión evidente en euskadi

a través de aquella iniciativa que ya se debatió aquí reconocer públicamente el trabajo indispensable que realizan los empleados públicos

tres semanas en aquel debate

y el partido socialista de euskadi firmaron una transaccional de tres puntos dos de los cuales upyd también apoyó en concreto

muestra su reconocimiento a la labor desempeñada por las personas que trabajan en la administración publica

en la prestación de los servicios públicos de la comunidad autónoma de euskadi votamos nosotros también

punto dos el parlamento vasco rechaza las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de españa y que inciden injustamente en los derechos laborales y salariales de las personas trabajadoras de la administración pública de la comunidad autónoma de euskadi también votamos a favor de este punto

en esta transaccional que ambos partidos firmaron incluían un tercer punto que decía lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en el uso de su capacidad de autogobierno utilice todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para no tener que aplicar las medidas impuestas unilateralmente por el gobierno de españa

anunciada para el año dos mil catorce nosotros decíamos en aquel debate que nosotros queríamos saber y seguimos queriendo saber cuáles son esas medidas políticas y jurídicas que se plantea o dice que se plantea el gobierno vasco

la enmienda de totalidad que hemos presentado de todo esto y de la interpelación realizada por eh bildu hace dos semanas al consejero aquí presente y de la propia respuesta dada por el consejero

decía que ante esta situación ante estas medidas tomadas por el gobierno de españa se preguntaba qué se puede hacer ante esto y

y la segunda alternativa decía él intentar esquivar intentar impedir la aplicación de esa normativa a través de otros procedimientos pero esta es una vía que ya se ha ensayado en este parlamento este mismo parlamento decía

que pretende eludir esa normativa básica acogiéndose a títulos competenciales propios de la comunidad autónoma

de navarra sin embargo decía el tribunal constitucional en dos sentencias que le recomiendo que lea decía la portavoz de eh bildu

que autorice a adoptar esta medida en contra de las normas básicas del estado y terminaba diciendo que ante esto a mí no se me ocurre muchas fórmulas alternativas esto decía el consejero decía que no se le ocurrían muchas fórmulas

esquivar esa decisión del gobierno de españa para esquivar para no aplicar esa decisión injusta del gobierno de españa y de todo esto viene la enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad de tres puntos dos de los cuales son exactamente iguales transaccional firmada entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y que nosotros apoyamos reconocer la labor desempeñada por los empleados públicos

unilaterales impuestas por el gobierno de españa en el sentido de son decisiones tomadas injustas por el gobierno de españa y añadíamos y añadimos ahora un tercer punto proponemos instar al gobierno vasco

unilateralmente por el gobierno de españa como es el caso de la congelación salarial para el año dos mil catorce

las medidas concretas y su alcance así como las consecuencias jurídicas y políticas que de dicha decisión derivarse esta es la enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado dos puntos que ya se aprobaron en este parlamento hace tres semanas y un tercer punto que lo que pretende es transmitir digamos transparencia que si el gobierno vasco piensa tomar alguna decisión

para no aplicar determinadas decisiones del gobierno de españa simplemente se pase por este

y explique a los grupos parlamentarios cuáles van a ser esas medidas y tal como se dice aquí cuáles van a ser las consecuencias jurídicas y políticas que de dicha decisión

gracias presidenta buenos días señorías el salario es una de las variables más importantes que hay en la economía y desde luego es la variable que mejor perciben los trabajadores porque

no de los índices de producción industrial del pib la variable salario es la que percibe el trabajador directamente

de la evolución de los salarios en la economía desencadenan efectos múltiples en un sentido o en otro en caso de que aumenten los salarios por supuesto los asalariados están muy contentos aumenta el consumo y se reduce la morosidad lo cual es un dato positivo

y cuesta más también reducir los índices de paro sin embargo veremos que todas las políticas que han traído hasta aquí esta pérdida de poder adquisitivo

estas políticas que han traído como digo esta pérdida este empobrecimiento de los salarios han disminuido los mismos y sin embargo

insistentemente diciéndonos que son que parecen irreductibles por lo tanto algo parece que no funciona en estas políticas de acortar abaratar los salarios

no parece que de momento haya una relación de causa efecto en la defensa de esos planteamientos sobre la pérdida de poder adquisitivo

limitado al ámbito del sector público realmente hay muchos informes que hablan de esto o sea hay informes de todo tipo si bien es verdad que en el ámbito vasco concreto no hemos visto alguno solvente hay de varios tipos yo he tenido que acudir a algunos de ellos para

perdieron un seis coma cinco por ciento según algunas fuentes porque esto del manejo de datos ya saben ustedes que está sujeto también a las fuentes que uno maneja

en el dieciséis coma seis por ciento por debajo del salario medio europeo la moción de bildu plantea analizar y cuantificar en cuánto ha quedado esta pérdida en relación a los empleos públicos por lo que además de las congelaciones salariales o reducciones en su caso también hay que tener en cuenta la inflación y habría que tener en cuenta también el aumento de horas de trabajo por lo cual a un salario constante y aumento de horas

sin embargo nosotros entendemos que a la hora de hacer este tipo de análisis circunscribirlo al sector público pues hombre es un agravio comparativo con el resto de la sociedad porque es que la devaluación de los salarios ha afectado prácticamente a toda la sociedad a toda la sociedad prácticamente digo

por esta inversión de las rentas como luego explicaré por ejemplo en el ámbito vasco algunos datos que sí que podemos manejar sabemos que entre el segundo trimestre de dos mil nueve y el mismo período de este año las retribuciones crecieron en la comunidad autónoma vasca un uno coma cincuenta y cuatro por ciento

el deterioro se ha acelerado en el último año en que los salarios en este caso se han reducido el uno coma dos por ciento mientras que los precios han subido el tres coma cinco es decir una pérdida de poder adquisitivo de

ha corrido la misma suerte que la de los trabajadores autónomos además de eso están los costes salariales no ordinarios es decir por ejemplo materia de despidos se ha abaratado los despidos aproximadamente un veintitrés coma dos por ciento y otros costes salariales no ordinarios

arrojan un descenso de un veinte coma seis por ciento pues tienen que ver con los recortes en los salarios reducción o eliminación de pagas extras etcétera de manera que

la devaluación y la reducción del poder adquisitivo bien por reducción de los salarios bien por la inflación

a todo el conjunto de la sociedad sin embargo la parte más sustancial de su propuesta es la que plantea no solamente hacer el informe sino adoptar medidas y ahí es donde ponen el dedo

porque claro en este momento el discurso político es sobre todo un ejercicio de fe porque consiste básicamente en creer

el alumbramiento de un nuevo amanecer o sea a partir de ahora todo va a ir muy bien estamos ya recibiendo noticias del más allá que nos dicen que esto tiene una pinta formidable

entonces como digo las rentas del trabajo las rentas del trabajo han ido disminuyendo

a tal punto de que por primera vez la participación de las rentas empresariales y de la propiedad en el producto interior bruto

en relación un cuarenta y seis coma uno por ciento las primeras

por ciento las rentas del trabajo cuando solo un año antes la remuneración de los asalariados en el pib suponía el cuarenta y siete coma cinco del pib y

esa situación y claro ustedes plantean medidas

lo hacen además en tono imperativo es decir qué medidas permitirán al gobierno y claro hoy en día no hay ningún responsable político ni financiero que sea capaz de decir qué medidas hay porque la sociedad y sus rectores están en el aturdimiento total es decir sabemos que hay una situación difícil

y por lo tanto aumentar el consumo pero lógicamente eso nos va a traer unos déficits aumentos del endeudamiento que por cierto también las medidas contra el déficit no han dejado traer aumento del endeudamiento pero bueno es que es todo así

es que es un agravio comparativo que un estudio de esa naturaleza se circunscriba al sector público por mucho que lo merezca realmente pero nosotros entendíamos que un análisis de estas características habría que hacerlo extensivo al conjunto del tejido productivo y por eso nuestra enmienda lo que plantea es que

en el conjunto y por sectores de forma desagregada para saber y no lo pone en nuestra enmienda pero también sería interesante aunque más costoso hacerlo de forma territorializada porque

es desigual por cuencas o comarcas la suerte que corren los asalariados y también las personas que están en el paro los índices varían mucho de unas zonas a otra y por lo tanto aunque no lo mencionamos también sería conveniente que tuviera esa variable territorial un análisis de esa naturaleza otro aspecto

que la actualización de los salarios no sea tal es la paralización de la negociación colectiva nosotros le hemos instado al gobierno en sucesivas ocasiones a que promueva a través del diálogo social las mimbres para tratar de que esa negociación colectiva

algo de actividad pero el gobierno ha afirmado que esa misión a día de hoy es imposible y que

por lo tanto nuestra enmienda se diferencia de su moción básicamente en esta cuestión que lo hacemos extensivo al conjunto

las medidas que se hubieran de adoptar no serían las mismas es decir medidas a adoptar para que recuperen el poder adquisitivo los trabajadores del sector público pues ya le digo yo una aumentar la presión fiscal pero claro eso iría en detrimento de otros trabajadores

que ser en el conjunto de la sociedad estrategias generales y por supuesto pues en fin

si no hay nadie capaz el gobierno no va a ser capaz de establecer las medidas que atinen con

podríamos establecer modelos econométricos teóricos que dijeran bueno para obtener la recuperación del poder adquisitivo perdido para lograr tal se tienen que dar estas condiciones y por lo tanto fijar a partir de ahí qué acciones a seguir podrían seguirse para llevar a cabo

teóricamente alcanzar esos objetivos eso es lo que nosotros hemos hecho a diferencia de lo que plantea la moción luego respecto de upyd que también es el otro enmendante y no se encuentra en la sala decir que bueno pues en fin como no está no le diré nada esperaré a

buenos días a todos bien como yo creo que todos hemos dicho volvemos a debatir la cuestión de las retribuciones de los funcionarios públicos y el debate que se ha celebrado aquí que se va a celebrar aquí

a la que mantuvimos pues como se ha dicho aquí hace tres semanas en esta cámara desde aquí quiero dejar claro porque

que desde luego desde el grupo parlamentario popular queremos reconocer

salir de la crisis nosotros somos plenamente conscientes

los efectos de la crisis y que por lo tanto gracias a ellos gracias también a su esfuerzo conseguiremos salir esperemos que más pronto que tarde

vivir los trabajadores públicos están siendo como digo una parte activa y están realizando un ejercicio de responsabilidad colectiva al aceptar unos ajustes necesarios

tenemos el pleno convencimiento y esto no es cuestión de fe señor itxaso

va a servir para que este país recobre lo antes posible la senda de la recuperación económica

para tratar de lograr equilibrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit anuales fijados por nuestros socios europeos pero también tenemos que ser conscientes que los funcionarios públicos

dichos objetivos sería negar la evidencia sino reconociéramos que los funcionarios y funcionarias vascas tienen unas condiciones laborales mejores

en aspectos como la seguridad y la estabilidad laboral la flexibilidad de sus horarios o determinadas compensaciones económicas que son ajenas al resto de la ciudadanía y también

fueron superiores a los incrementos del ipc y superiores por tanto a los de la mayoría del resto de ciudadanos y por tanto dejando

ese esfuerzo nosotros creemos que se ha solicitado porque también se encuentran en mejor disposición que otros colectivos para poder ayudar a superar la crisis económica

la proposición plantea una serie de cuestiones que todos los aquí presentes con independencia del sentido de nuestro voto

de que no creemos que vaya a llevarse a cabo porque no sé si sabremos si lo va a llevar a cabo el gobierno del partido nacionalista vasco pero desde luego los gobiernos del grupo proponente

donde gobiernan no las llevan a cabo eso sí que

y lo décimos porque el plan de medidas solicita que solicita la proposición

creo que se lo puede hacer el señor itxaso que ya le ha dado los datos eso sí le ha dado una serie de datos

cuando ustedes gobernaban aquí y en el resto de españa de pérdida de poder adquisitivo pero hasta donde este grupo parlamentario conoce y usted nos lo dirá señora zulaika

una medida similar y en todas aquellas afirmaciones que usted ha hecho de adelgazamiento de la administración de amortización de puestos de trabajo ha hecho todo lo contrario de lo que usted

y nos parece todavía menos riguroso plantear este tipo de iniciativas a sabiendas de que tienen un recorrido político muy reducido se presentan además sin aportar lo que es más importante ni un solo dato sobre el impacto económico que tendría esta medida en las arcas públicas quiero recordarle que euskadi

y entendemos por tanto que una iniciativa que pretende que los funcionarios públicos puedan recuperar el poder adquisitivo minorado durante estos últimos años debería cuantificar el impacto presupuestario que ello conllevaría y además de todo ello como todos lo aquí presentes somos perfectamente

importante la iniciativa debería explicitar y concretar qué medidas complementarias establecería para mantener el equilibrio de las cuentas públicas y cumplir con el objetivo de déficit

no cumplir ese objetivo y punto porque si no

aumentando la deuda pública que según los datos correspondientes al segundo trimestre del presente ejercicio supera ya el doce por ciento del pib o si lo piensa cubrir

o a base de ajustes presupuestarios lo que no vale es plantear medidas sin que estas vengan acompañadas de su modelo de financiación y aquello responde a un modelo de hacer política demagógica facilona con escaso rigor y como usted ha dicho hipócrita el partido popular apuesta por sentar las bases que propician la recuperación económica de nuestro país para que a partir de ahí podamos ir de forma ir de forma paulatina incrementando los niveles retributivos de los funcionarios

habrá creación de empleo y si hay creación de empleo habrá más contribuyentes y por extensión mayores ingresos para las arcas públicas que entre otras cuestiones permitirán también incrementar las retribuciones del conjunto de los funcionarios públicos y no señor itxaso no se trata de fe

no pero no podemos ocultar y así lo ponen de manifiesto todos los organismos y todos los indicadores económicos que se perciben síntomas de recuperación

de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores la mayor pérdida de poder adquisitivo que tiene un trabajador señor itxaso es la pérdida del empleo y el mayor destructor de empleo de este país fue el gobierno del señor zapatero que destruyó

y un buen ejemplo de que como digo sin embargo y sin hablar de brotes verdes como le digo pero sí que se perciben síntomas de recuperación un buen ejemplo

desde que existen series históricas el desempleo ha descendido por tanto en lo que vamos a seguir es en estar volcados en sacar a este país de la crisis económica que aún estamos viviendo vamos a perseverar en profundizar en las medidas que

y vamos a empecinarnos de forma obstinada en que el conjunto de los españoles funcionarios incluidos

funcionarios incluidos puedan abrazar en un futuro próximo la normalidad económica perdida en estos últimos años tengan por seguro por mucho que a ustedes les parezca lo contrario que el gobierno de mariano rajoy no ha adoptado muchas de las medidas

tengan por seguro que al gobierno no le gusta bajar el sueldo de los funcionarios no tiene el objetivo de fastidiar al cuerpo de funcionarios públicos y tengan por seguro también que el gobierno ha impulsado determinadas decisiones pensando exclusivamente en el interés general del país

expresando y pidiendo a todos los grupos que hagamos un ejercicio de responsabilidad de mesura de rigor y de prudencia política para que tomando como base estos principios podamos en un futuro próximo devolver a los funcionarios el esfuerzo realizado durante estos años que desde aquí

si el consejero de salud felicita a los trabajadores está en todo su derecho de hecho él mismo

y en este gobierno la mayoría de los consejeros también son empleados públicos están en todo su derecho a felicitar a los trabajadores públicos nork esan dezake gobernuak ezin duela hori egin

eta gustatuko litzaidake medidas políticas y jurídicas aipatzen genuenean azaltzea

que es de sobra conocida a lo que me estoy refiriendo se trata simplemente de llevar a cabo una negociación política

las mismas medidas que en otras comunidades autónomas porque la situación económica es diferente y simplemente por respeto a nuestro autogobierno

de seguir recurriendo a los decretos leyes ante el tribunal constitucional tal y como está previsto

es posible dar pasos concretos y tomar medidas concretas para recuperar ese poder adquisitivo no solamente lo digo yo

en la que se presentan el proyecto de presupuestos

la situación económica fuera otra que no lo daba por imposible entonces medidas hay y hemos visto que en algunos sitios se han llevado a cabo esas medidas concretas no quiero volver

y eh bildu en gipuzkoa en la diputación de gipuzkoa ha hecho no sé qué no

también lo ha hecho también lo hizo en el ayuntamiento de durango con una subida salarial de entre un cuatro y un ocho por ciento hay que recordar

es del pnv entonces allí donde se quiere realmente se toman medidas

eso lo saben ustedes también ahora si el problema es decidir qué medidas tienen que ser esas no se preocupen que nosotros

ya les ayudaremos a dilucidar todas esas medidas respecto al señor itxaso sí que me gustaría decirle que usted ha dicho que el dirigir la moción solamente

podría ir en detrimento del sector privado de los trabajadores del sector privado nosotros entendemos que eso nunca va a ser así porque la mejora como he dicho en la primera intervención de las condiciones laborales de todos los empleados públicos

van directamente proporcional en la calidad de los servicios públicos de los que nosotros también somos

por lo tanto creemos que no y por supuesto que estamos de acuerdo en

no es algo que atañe solo al sector público por supuesto que no por supuesto que le atañe a toda la sociedad

destruye empleo directamente porque si el consumo baja

se va a destruir empleo además hemos dicho que también en la administración pública se está destruyendo empleo la administración tiene que ser referente porque en el sector privado se toma referencias sobre todo en épocas de crisis sobre todo cuando las cosas van mal y les dicen allí donde si los funcionarios se les bajan el sueldo a vosotros también y bastantes bajadas están teniendo y quiero decir con esto que

en definitiva que la pérdida de las condiciones laborales

de la calidad de los servicios públicos y yo creo que este gobierno no lo tiene que permitir tampoco al señor orbegozo le quiero decir que tampoco con nuestra propuesta lo que proponemos

lo que pedimos es que se haga un informe para saber realmente cuál es la pérdida real de los empleados público se puede calcular que es entre un veinte por ciento o un treinta por ciento

más cerca del veintitrés por ciento o veinticinco por ciento pero queremos saber realmente cuál es esa pérdida real el señor itxaso ha dicho que hay informes a nivel estatal nos gustaría tener uno propio de aquí

todo el año que viene no hacer una planificación para ver como se puede ir recuperando ese poder adquisitivo y como digo el consejero erkoreka ya de alguna forma dejaba caer

eso es lo que queremos pedir con esta iniciativa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea mistoa

el hecho de que este debate traiga causa de otros debates anteriores no quiere decir que a la hora de enfocarlo como tema en concreto uno tenga que seguir los criterios de lo que se habló en su momento sino

a nosotros nos ha parecido muy oportuno traer una iniciativa que hable de la pérdida de poder adquisitivo aunque estaba ceñido al sector público nos parece que es un análisis importante

cómo de qué manera podemos salir ese es el debate señora llanos usted dice que nada peor que perder el empleo peor que el poder adquisitivo hombre podría decir que perder la vida también es lo peor de todo pero es que realmente ustedes para justificar las políticas solo pueden echar mano de zapatero y se lo voy a decir lo que le dije ayer a su compañera garrido

porque retiró las donaciones anónimas a los partidos y eso es lo que no le van a perdonar nunca

de por vida usted señora llanos cuando da datos es muy curioso porque si se trata de criticar la postura del gobierno vasco los datos siempre alumbran una situación horrorosa

por lo tanto esa bipolaridad política no me sorprende y por lo tanto que tengan ustedes dificultades para comprender que la contabilidad se lleva una sola vez y no dos

cuando se trata de analizar una cosa esos datos hay que leerlos optimistamente y cuando hay que analizar otras cosas esos mismos datos u otros parecidos los que vengan a mano

porque hay políticas de las cuales los socialistas también somos corresponsables yo no voy a eludir una evidencia pero se han impuesto políticas que han podido con todos nosotros y que han arrojado estos resultados y es de lo que se trataba de hablar aquí

no de echar culpas a nadie sino de ver en cuánto en cómo y de qué manera

nadie lo sabe pero habrá que plantear escenarios horizontes cuantificarlos establecer hipótesis ideales

nuestra enmienda y señor maneiro usted ayer en prensa decía que echaba de menos que el partido socialista había renunciado a hacer oposición al partido nacionalista vasco mientras tanto en la comisión de empleo había dos empates que no se pudieron resolver por su ausencia yo le pido

para que realmente coadyuve con nosotros a hacer oposición al gobierno nada más y muchas gracias

por partes al partido nacionalista vasco que únicamente ha explicado bueno se ha referido a las palabras del consejero erkoreka

a ver cuáles son esas posibles fórmulas sobre esa seguridad jurídica y sobre todo sobre

bien importante a la representante de bildu es que no me contesta nunca claro yo entiendo que no me conteste porque es que no tiene contestación

pero yo le voy a volver a hacer las preguntas porque como seguro que vuelven a traer el debate aquí que no entiendo porque si usted dice en su réplica que el señor erkoreka ya lo dejó ver

según usted que se iba a recuperar el poder adquisitivo de los para qué trae la iniciativa y luego hablan de que los demás traemos iniciativas por traer

pero yo le vuelvo a hacer la pregunta porque ya le digo como lo volveremos a debatir donde gobierna

van a aplicarlo y para aplicarlo de dónde van a sacar el dinero de dónde porque se lo he dicho

y no es cuestión del y tú más es que con ustedes es

que para mí no tengo porque ustedes han tenido como les digo en orduña

las que eran había que reducir un cinco por ciento y entonces pues había que amortizar puestos de trabajo y había que

habla usted de precarización laboral pues oiga si me dice que no es precarización laboral

a una serie de asesores trabajando sin cobrar un duro y sin cotizar a la seguridad social ya me contará usted cómo le llama a eso si eso no es precariedad laboral eso también en el mismo ayuntamiento que es experto en este tipo de cosas yo no sé si en la siguiente legislatura a este alcalde le van a dejar ustedes seguir presentándose por bildu porque claro viendo lo que aquí defiende y viendo lo que hacen luego pues no lo sé muy bien

no le voy a hablar de demagogia usted vive en un mundo paralelo de verdad vive en un mundo paralelo

perder el empleo pero yo creo que si a un trabajador usted le dice qué prefiere

usted mismo se puede

nos parecía una falta de rigor de verdad que la suya ya es

es inviable y es absolutamente desproporcionada es fruto de eso que le digo en muchas ocasiones

permítame que es una expresión bastante poco plausible para utilizarla aquí pero como usted la ha utilizado

sino porque es que de verdad se lo digo señor itxaso es que recurrir a zapatero no es cuestión de encebollamiento es que es cuestión

es que se hace absolutamente imposible es que deviene

que ustedes ya hasta frivolicen con él y mire y utilizando las ensaladas nosotros no estamos encebollados con zapatero pero los que están avinagrados con las políticas del señor zapatero son el conjunto de los ciudadanos españoles

que dejó lo que dejó y yo de verdad señor itxaso

aquí lo ha dicho en su primera intervención ha hablado de pérdidas de poder adquisitivo y ha hablado de unos ejercicios en los que gobernaban ustedes y se lo he dicho en mi primera intervención aquí

brillantes para la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios públicos

es que se lo digo siempre pero de verdad que es una desgracia para este país para españa y para euskadi que ustedes todas las ideas

solo se le ocurran cuando están en la oposición nada más muchas gracias eskerrik asko

pues que se haga un informe para saber la pérdida real de todos los trabajadores del sector público hori zen zuek eskatzen zenutena

nos parecería una iniciativa interesante y de la que resultaría una fotografía muy interesante

ya le he explicado también a ver por qué le corresponde al gobierno vasco y no a otra institución o conjuntamente con todas las instituciones llevar acabo ese informe

que ha dicho que este gobierno no tenía ideas no tenía medidas

sí que las hay lo que pasa que no se las dejan aplicar entonces habrá que

no es que no haya ideas o medidas sino que toda esa normativa básica aprobada vía decreto ley eta besterik gabe mila esker